señorías hoy vamos a volver a hablar de los trabajadores sin garantías en sus derechos vamos a hablar de fraude laboral

de empleo sumergido y de jornadas abusivas vamos a hablar de todas esas infracciones que se cometen contra los derechos laborales y que son posibles

no consideren la dignidad de quienes sacan adelante sus empresas sino también por la ausencia de recursos administrativos suficientes para impedirlo

y del que nunca oímos hablar a algunos que tienen esta palabra en la boca para restringir derechos es un fraude que nosotros queremos atajar sin excluir a nadie solamente reforzando los mecanismos de control

hoy no solo cubrir las vacantes existentes sino también una negociación del gobierno vasco con el gobierno de españa para aumentar el servicio

de aquello que aprobamos hace tres meses en esta misma cámara de aquello que convinimos que era necesario para poner pie en pared ante los abusos laborales

hace ahora tres meses y que una vez más no ha cumplido

el siete de noviembre a instancias de mi gobierno acordamos un plan específico de refuerzo de inspección de trabajo

hacerlo en tres meses y con un objetivo reducir al máximo las tasas de precariedad en el trabajo y las irregularidades en las contrataciones

ya en las últimas sesiones este gobierno no entiende para qué hay empleados públicos

en este momento de crisis y precarización esos inspectores deben velar por el cumplimiento de la normativa vigente y es por esa razón por la que hay que cubrir

pero también es igualmente importante aprobar cuanto antes desde función pública la ampliación de la relación de puestos de trabajo

en puestos de inspectores de trabajo como prometió en este pleno el anterior consejero de empleo y políticas sociales aburto el veintiocho de noviembre del año pasado cuantos más efectivos tengamos mejores serán los resultados obtenidos desde la inspección de trabajo

inspectores más vigilancia contra los infractores

en el monográfico de lucha contra el paro y la pobreza pero antes de hoy el veintiocho de noviembre pregunté al consejero de empleo y políticas sociales al señor aburto cómo iba a cubrir todas las plazas de inspectores que existían en el momento de la transferencia es decir hecha la foto a uno de enero

porque desde esa fecha habían quedado seis vacantes eran pues seis plazas menos por jubilaciones y traslados

y gipuzkoa solo se ha cubierto desde entonces una por comisión de servicios y no se ha convocado ningún concurso para la cobertura de las cinco restantes

no se pueden cubrir de manera autónoma por nuestra administración sabemos que solo pueden ser cubiertas mediante la inclusión de las mismas en los concursos a nivel nacional pero sabemos también que su inclusión en concurso público se ha de solicitar anualmente por parte del gobierno vasco a la dirección general de la inspección de trabajo

tal como señala el anexo seis del acuerdo complementario uno del acuerdo de traspaso a la comunidad autónoma vasca de la inspección de trabajo anexo que se refiere

y sabemos que se ha perdido un año porque desde la aprobación de la relación de puestos de trabajo a finales del dos mil trece hasta la fecha el gobierno vasco no ha solicitado la inclusión de esas vacantes a cubrir en puestos de inspectores de trabajo en la comunidad autónoma vasca

el gobierno vasco no ha conseguido que madrid saque todavía el concurso que nos permite en el país vasco cubrir los recursos humanos necesarios que le corresponden para luchar

no hagan dejación de su responsabilidad como vigía de las condiciones de los trabajadores y no hagan dejación de sus competencias de autogobierno no podemos más tiempo es vital esa convocatoria es vital para vigilar las condiciones en las que se trabaja en euskadi y es vital para impedir fraudes y como no podemos esperar más queremos que se solicite a madrid

las cinco plazas vacantes actualmente y además que se pida que se cubran en resultas las plazas libres que pueden quedar en el país vasco tras el concurso por movimientos nuevos

y que esas resultas se cubran con los inspectores que hubieran solicitado dichos destinos eso se puede pedir a la dirección general de la inspección de trabajo y si se pide

por movimientos nuevos de inspectores ahora destinados en nuestra comunidad que puedan ser trasladados a plazas existentes en el resto de españa incluida también cataluña

en el país vasco y en cataluña pero ahora deberíamos ir más allá los socialistas vascos

haga gala de defender el autogobierno con hechos queremos que el departamento de empleo y políticas sociales

el número de plazas de inspectores transferidos porque es de vital importancia para conseguir los mejores resultados de la actuación de la inspección de trabajo y también con el citado mandato del siete de noviembre de este parlamento para que este gobierno elabore ya el comprometido plan específico para el refuerzo de la inspección de trabajo

suficientes orientados a la lucha del empleo sumergido las jornadas abusivas

autónomos y cualquier otro tipo de vulneración de la legalidad de momento

como está incumplido de momento el anuncio del consejero aburto el veintiocho de noviembre aquel por el que prometía una ampliación de seis plazas más

con nuevas comisiones de servicio o en su caso esperar a nuevos concursos pero que deben de ser aprobadas por función pública del gobierno vasco con carácter previo para que esto sea posible a fecha de hoy todavía no se han aprobado estas plazas

en el momento de la transferencia y para eso sí tiene facultad el gobierno vasco y todavía sigue pendiente de que se dé ese ok hacer efectuar esa ampliación desde función pública es por ello por lo que mi grupo parlamentario los socialistas vascos hemos presentado esta proposición de ley para en primer lugar el parlamento vasco tenga en cuenta en el plan de refuerzo de la inspección de trabajo al menos cubrir todas las plazas

de trabajo de la inspección de trabajo y se efectúen las pertinentes negociaciones con el gobierno de españa para que a la mayor brevedad posible

para la cobertura de los puestos de trabajo de las vacantes existentes en la actualidad pero también en segundo lugar el parlamento vasco inste al gobierno vasco ampliar el número de plazas existentes en la actualidad en la relación de puestos de trabajo

en puestos correspondientes lógicamente inspectores de trabajo con el fin de poder conseguir mejores resultados en los objetivos asignados a la labor inspectora

las jornadas abusivas los falsos autónomos y cualquier otra vulneración de la legalidad señor toña su antecesor le ha dejado

que le afectan a su gestión los socialistas queremos que usted actúe

pero tiene encomendadas tareas tremendamente sensibles trabajar por el empleo es favorecer las condiciones para nuevas oportunidades y es también vigilar para que nadie se aproveche de las consecuencias de esta larga crisis para abusar de las condiciones en las que se trabaja

todos los recursos posibles le pedimos que los ponga en marcha refuerce la inspección de trabajo cubra las vacantes por un lado y negocie aumentar las plazas y preste así un servicio completo a los trabajadores

de todas sus competencias de todo el autogobierno y de toda su capacidad negociadora a esta iniciativa solo se ha presentado una enmienda a la totalidad por parte del grupo eh bildu mi grupo

mantener la iniciativa presentada en un momento inicial con el fin de no desvirtuarla porque en un primer lugar

que ya a mi juicio está incluida dentro de la propuesta que nosotros

la transferencia de la seguridad social que lo único que hacía era distorsionar lo que es el objetivo

de esta iniciativa señorías esta proposición no de ley es muy importante es por ello que pido a todos los grupos parlamentarios de la cámara
que voten a favor de la misma nada más y muchas gracias eskerrik asko

por el grupo socialista nos gustaría analizar o explicar la situación en la que se encuentra la inspección de trabajo y seguridad social en el país vasco

es el resultado de una mala transferencia y de una mala gestión del servicio que se prolonga hasta hoy desde el momento en que se produjo la transferencia hasta el día

diez en gipuzkoa y seis en álava antes de la transferencia cuando la inspección era estatal

en gipuzkoa y siete en álava es decir la propia transferencia de alguna manera mermó los efectivos dedicados a esta materia así mismo la estructura organizativa se redujo al mínimo absoluto un jefe por territorio histórico una vez realizada la transferencia se plantearon todo tipo de problemas por parte del departamento de función pública y por parte también del estado en primer lugar la rpt no estaba aprobada

un nivel de destino definitivo para las plazas estas no podían salir a concurso aunque sí salieron en cataluña comunidad que se encontraba en la misma situación que euskadi en segundo lugar como solución alternativa

a una plaza aquí sin embargo el departamento de función pública del gobierno se negó alegando que sin la rpt aprobada no se podían conceder comisiones

pero lo realmente grave es que cuando cambia el gobierno resulta que el departamento de función pública dice que sí se pueden cubrir las plazas por comisiones de servicio entre tanto entre inspectores que se van en concursos nacionales alguno que se jubila bajas maternales

seis en gipuzkoa y cuatro en álava a todo ello se unió el hecho de que pretendían suprimir los despachos de los inspectores en gipuzkoa aprovechando el cambio de ubicación de la inspección el mes de noviembre de dos mil catorce

una contundente nota de prensa en la que decía lo siguiente en el mes de febrero de dos mil doce denunciábamos la improvisación

a la hora de realizar la transferencia a euskadi hemos continuado ejerciendo nuestra labor de la mejor manera posible

después de aprobar la relación de puestos de trabajo a finales del año dos mil trece parece que ya han hecho todo lo que tenían que hacer y de facto están desmantelando la inspección de trabajo

dedicados a materias competencia de la comunidad autónoma en gipuzkoa catorce y en álava siete

diez en gipuzkoa y seis en álava en la actualidad y sin que este gobierno haya hecho nada para evitarlo

gipuzkoa con seis y álava con cuatro decía esta nota de prensa es un auténtico organizativo que es imputable directamente a los más altos responsables de este gobierno que son incapaces de mantener una mínima gestión en un momento de máxima conflictividad social donde constantemente se nos exigen intervenciones rápidas y de una envergadura tal

como por la inexistencia de un mínimo cuadro organizativo decía también la nota de prensa la última barrabasada de este gobierno ha sido la de decidir que los inspectores de trabajo y seguridad social del país vasco no necesitamos despachos para realizar nuestra labor concretamente se ha decidido

a las instalaciones de la delegación territorial en un espacio totalmente diáfano y abierto ni siquiera la jefa de inspección territorial va a disponer de despacho en esta situación es evidente que no se va a poder garantizar la confidencialidad necesarios pretenden que trabajadores empresarios sindicatos y ciudadanos en general comparezcan ante los inspectores en un espacio al público aportando documentos y pruebas que en la mayoría de los casos están protegidos por la ley de protección de datos continuaba esta nota de prensa

es el departamento de hacienda y finanzas que ha hecho caso omiso de todas y cada una de las explicaciones y peticiones que se han dirigido desde el departamento de empleo y desde la subdirección

es el desmantelamiento progresivo y sistemático de la inspección de trabajo y seguridad social en el país vasco el único organismo competente para fiscalizar y exigir de oficio y de manera imperativa el cumplimiento de las normas de orden social en el territorio y continuaba y terminaba esta nota de prensa hemos mantenido múltiples reuniones con altos responsables de este gobierno barajado seriamente la posibilidad de una huelga total indefinida la verdad es que el colectivo está cansado y harto esto es lo que decía el colectivo

se ha conseguido que los inspectores de gipuzkoa tengan despachos ya que el consejero decidió a ultima hora que la nueva ubicación de la inspección vasca fuera en el mismo sitio que la estatal lo que implica

y que de alguna manera se asumiera como un compromiso de gobierno la reestructuración de la inspección en fin una pequeña mejora un pequeño paso en la buena dirección según nos informa la propia asociación los problemas gravísimos que afectan hoy mismo a la inspección transferida son los siguientes falta de efectivos en todos los territorios con una situación especialmente grave

el concurso nacional de traslados no acaba de convocarse y tampoco se conceden comisiones de servicios

de normalidad falta de estructura directiva intermedia debido a la transferencia y a las propias decisiones de este gobierno incapaz de corregir las deficiencias de la transferencia falta de coherencia y claridad en las relaciones con la inspección estatal y en la propia organización interna de cada inspección territorial en definitiva falta de un modelo claro de inspección de trabajo descentralizada

por la inspección de trabajo esta es la situación real en la que se encuentra la inspección se transfirió por motivos puramente políticos

así por motivos puramente políticos en donde no se tuvieron en cuenta criterios técnicos ni jurídicos ni se planteo la eficiencia o no de la transferencia ni la necesidad real de que euskadi asumiera este servicio ni los efectos sobre los ciudadanos

estamos y nos encontramos con los resultados por todos conocidos y a ello se une en fin una voluntad política de desmantelamiento y neutralización de la inspección según ha denunciado la propia asociación en conclusión una verdadera tanto en lo que se refiere a la transferencia producida como en lo que se refiere a la gestión y a la toma de decisiones posteriores en fin hay que corregir esta situación urgentemente ya que estamos hablando de un servicio esencial

las jornadas abusivas los falsos autónomos y otras vulneraciones de la legalidad en fin por esto votaremos a favor de la iniciativa socialista a la espera de que sirva para que se tomen cuanto antes las decisiones

para dar la vuelta y corregir esta gravísima situación gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria ruiz andrea zurea da hitza

gracias presidenta señorías el grupo popular va a votar a favor de la proposición no de ley del partido socialista

parece ser que la iniciativa de la señora sánchez va a concitar un apoyo

que tratándose de trabajo que es la gran preocupación y la gran prioridad de los vascos es algo importante y recobra mayor valor si cabe

las jornadas abusivas las picarescas laborales la tergiversación del trabajo de los autónomos la vulneración de la ley son funciones que deben contar con toda la atención por parte del gobierno vasco y no parece de momento sea el caso a tenor de las declaraciones que

de la asociación de inspectores de trabajo y seguridad social del país vasco por eso

más ejecutivo en definitiva es lo que entiendo que promueve esta iniciativa si no me corrige la proponente porque el tiempo se les está echando encima a los responsables del gobierno vasco desde que se transfiriera la competencia que se hizo

auspiciada con gobiernos socialistas tanto en euskadi como en españa

burocracia administrativa con las connotaciones peyorativas nunca mejor traídas a colación nos sitúan en el pleno actual instando

como vamos a votar a favor y vamos a coincidir con el partido nacionalista vasco en esta votación

incumplimientos de compromisos que también se los ha recordado la señora sánchez en los retrasos en la gestión deficiente inconclusa del anterior consejero de empleo y asuntos sociales digamos que

las inspecciones ni las de las rentas de garantía de ingresos ni tampoco las inspecciones de trabajo

no nos beneficia en absoluto prestar peor servicio a los ciudadanos ejerciendo nuestras competencias

que cuando esa transferencia no era nuestra no la ejercíamos

por reducir a la mitad a los inspectores de trabajo les han acusado de falta de planificación de desmantelar el servicio desde que se asumiera la competencia confiemos que con la aprobación de esta iniciativa demos el impulso definitivo para que la inspección de trabajo cuente con los recursos humanos

para desempeñar su labor que tendría que ser como mínimo tan eficiente como lo haya sido o lo haya podido ser antes de la transferencia competencial una

en el país vasco no puede prestar un servicio al ciudadano de calidad y esto también se puede considerar un recorte social me pregunto si va a escudarse el gobierno vasco en la maraña administrativa y

para desarrollar la nueva competencia de manera eficaz y adecuada si el gobierno estuviese siendo más diligente hoy no estaríamos

es una contradicción nacionalista reivindicar y asumir competencias y luego relajarse a la hora de ejercer el autogobierno

en los matices cuando lo que se va a alcanzar es un alto grado de consenso

no de ley confiando que con ello se resuelvan los problemas
y deficiencias de la inspección de trabajo en euskadi muchas gracias eskerrik asko

moduan en el pleno monográfico sobre pobreza celebrado el pasado siete de noviembre efectivamente se aprobó una propuesta de resolución que instaba al gobierno a elaborar en tres meses un plan específico para el refuerzo de la inspección de trabajo con recursos humanos y materiales suficientes orientados

señora sánchez como usted bien sabe este gobierno está encima de esto desde que llegó pero para materializarlo era imprescindible aprobar una rpt la competencia se transfirió el uno de enero del dos mil doce y al finalizar la legislatura socialista aún no había rpt

el gobierno lo ha hecho lo ha hecho y no ha hecho dejación de nada señora sánchez ya en el pleno de control del pasado uno de diciembre el consejero aburto dio cumplidas explicaciones sobre el refuerzo del servicio de inspección

dabilelako eusko jaurlaritzako enplegu eta gizarte gaietako saila por tanto señora sánchez siempre que inste al gobierno vasco a hacer algo

como le dijo el consejero aburto el departamento de empleo y políticas sociales está trabajando en la elaboración de un plan específico para el refuerzo de la inspección de trabajo

por un lado medidas de refuerzo de la plantilla y por otro medidas de refuerzo de la actividad respecto a la plantilla es exactamente la misma que se transfirió a euskadi en dos mil doce no se ha reducido en absoluto es cierto

que como usted muy bien conoce al tratarse de personal de habilitación del estado

y es preciso esperar a la convocatoria de concursos de traslados o de plazas de nuevo ingreso en el sistema de inspección de trabajo y seguridad social o bien solicitar comisiones de servicios a la administración del estado

para lograr cubrir las vacantes de manera temporal en tanto se articulan los procedimientos de cobertura definitiva de las vacantes y como usted conoce también

optar a cubrir las vacantes en las convocatorias que se llamen es necesario tener aprobada la rpt esta rpt del departamento de empleo y políticas sociales

en cuanto al refuerzo de la actividad se han adoptado medidas encaminadas a incrementar las intervenciones programadas

de fiscalización del cumplimiento de las normas laborales además se está diseñando y actuando en campañas específicas dentro de la estrategia

como las de detección del fraude en la contratación temporal y de incumplimiento en materia salarial este plan de refuerzo ya se estaba haciendo previamente a la propuesta de resolución que fue aprobada en el pleno sobre pobreza la proposición no de ley

solicita que se negocie con el gobierno del estado para que se lleve a cabo la convocatoria de concursos para cobertura de los puestos de trabajo vacantes en la actualidad y para ampliar el número de plazas existentes en la rpt en vigor incluyendo ambos aspectos en el plan de refuerzo ondo dakizunez

estatuko gobernuak eta eusko jaurlaritzak una vez aprobada la rpt

quiero recalcar que desde el momento de la transferencia la plantilla se mantiene si bien es cierto como se ha comentado que existiendo algunas vacantes

una vez aprobada la rpt como decía sería posible cubrir estos puestos con una convocatoria

el estado es más extensa el gobierno vasco tiene mucho interés en hacer esta convocatoria y que así el servicio de inspección quede dotado en las mejores condiciones para ello en diciembre dio a conocer un borrador de convocatoria con la intención de aprobarlo en el primer trimestre de dos mil quince enplegu eta gizarte

azaldu zuen baita efectivamente el consejero aburto dejó claro que el plan de refuerzo del servicio de inspección además de las medidas de refuerzo de la plantilla también prever esas medidas de refuerzo de la actividad para mejorar los resultados asignados a la labor inspectora tal y como también solicita la proposición no de ley que estamos debatiendo como también queda claro en su quehacer diario que este gobierno está dispuesto a hablar del gobierno del estado de este y de

el funcionamiento de las competencias propias pero yo me pregunto el gobierno del estado está tan dispuesto a hablar con el gobierno vasco para mejorar el funcionamiento de estas competencias

a hablar de las competencias recogidas en el estatuto de autonomía pendiente de transferir nosotros lo dudamos aún más

egingo dugu legez besteko proposamena sobre la solución que usted propone

en el segundo punto a nosotros sin duda también nos gustaría que la totalidad de la competencia de seguridad social estuviese ya en euskadi pero por desgracia no es así

ya sabe que hay que respetar la normativa vigente y en este punto yo no le voy a poner ejemplos de cómo ustedes se pliegan a la normativa vigente

ese punto segundo de su enmienda es un brindis al sol ojalá las competencias se pudieran asumir así si fuese así de fácil conseguir una competencia

no nos pondríamos ese ridículo plazo de seis meses que usted se pone ya lo hubiesemos hecho

al día siguiente de aprobarse nuestro estatuto nos ha costado y nos sigue costando gran esfuerzo que las competencias recogidas en el estatuto de autonomía de euskadi una ley orgánica del estado sistemáticamente incumplida por este estado decía que nos cuesta gran esfuerzo que las competencias nos sean transferidas pero aunque sea más despacio de lo que nos gustaría

este grupo parlamentario y todo el partido al que representa aquí ha venido trabajando

y en todos los lugares donde hemos tenido representación decía que ha trabajado persiguiendo conseguir las transferencias pendientes conseguirlas de la mejor manera posible para los intereses de la ciudadanía vasca

muchas gracias presidenta señora zulaika eh bildu

quería que en el gobierno vasco en un año aumentara en un tercio el personal de la inspección de trabajo pero

en nuestra proposición no de ley y le voy a hacer rápidamente la cuenta a la vieja si se transfirieron ciento cinco puestos de trabajo y

diez en gipuzkoa y seis en álava además del puesto de subinspector son treinta y siete si en esta proposición se están pidiendo que se cubran las cinco vacantes que hay ahora mismo más las seis más se prometió por el señor aburto estamos hablando de once plazas con lo cual eso cubre el tercio de las plazas y yo considero que no podemos esperar un año en su propuesta usted está diciendo que de aquí a un año es que lo que yo estoy diciendo es que no podemos tardar otro año más es que ya hemos perdido el año pasado entero qué vamos a perder este año entero otra vez no

es que haga a la mayor brevedad posible a mí el plazo de un año me parece una burrada es que es perder otra vez el año entero no me parece correcto su propuesta me parece muchísimo más correcta la propuesta que mi grupo el grupo socialista ha efectuado en esta materia pero además

y a mí no me gustan todos los totum revolutum yo he venido aquí a hablar

con la transferencia pendiente de la seguridad social porque es mezclar las churras con las merinas y a mí eso no me gusta entonces si yo estoy hablando aquí de la inspección de trabajo se presenta una iniciativa de la inspección de trabajo y no me gusta

porque aunque la inspección de trabajo tenga competencias en el área de seguridad social una cosa es la transferencia de seguridad social y otra cosa es la inspección de trabajo

en la misma iniciativa por otro lado señor maneiro le tengo que decir que la transferencia de la inspección de trabajo ha sido positiva dentro de nuestra comunidad autónoma y que además esta transferencia se produjo a principios de enero de dos mil doce de una forma ejemplar sin generar y sin generar ningún retraso que sufriera la ciudadanía ya me gustaría que otras transferencias se hubieran producido con la ejemplaridad que se produjo la transferencia de la inspección de trabajo en esta comunidad autónoma pero con independencia de eso lo que esta iniciativa trata de evitar en eso estoy de acuerdo con usted es que gota a gota

no se podían cubrir las vacantes que se iban produciendo hasta que no saliera la relación de puestos de trabajo

la gota a gota a gota a gota lo que puede llevar es al desmantelamiento de la inspección de trabajo transferida y eso precisamente es lo que pretende evitar la iniciativa que hemos presentado los socialistas vascos precisamente hoy aquí y la transferencia

no se realiza por cuestiones políticas es que la transferencia está recogida dentro de nuestro estatuto y nosotros dentro de nuestra legislatura lo que hicimos es conseguirla y hacerla efectiva ahora lo que toca es pelear porque precisamente

porque no se vayan cubriendo esas vacantes y además también planteamos que podemos mejorarla que ya que tenemos la promesa del señor aburto de ampliar en seis plazas más

utilicémoslo porque eso es lo importante y eso es lo que yo pidiendo y señor aiartza yo creo que lo que queremos es eso que se cubran las vacantes

el plan de refuerzo decía que se haría en tres meses y lo que yo estoy diciendo aquí en mi intervención es que esos tres meses ya han pasado y seguimos esperando y no se ha cumplido ya sé que tenemos que esperar a la aprobación de la rpt si es que yo lo he dicho en mi primera intervención y lo vuelvo

jurídicamente y técnicamente no se puede producir porque si no tienes una rpt no tienes la plaza para poderle asignar y poder entrar en un concurso lo que hayan hecho en cataluña si lo han hecho bien o mal es su problema no es el nuestro allí lo hicieron mal aquí se ha hecho bien eso es otra cuestión

sin más yo lo que creo es que como hemos dicho todos los grupos creo que esto es importante creo que esta iniciativa es importante

absolutamente de acuerdo y por tanto les pido a todos los grupos parlamentarios

de esta iniciativa porque el refuerzo de la inspección de trabajo para velar por el cumplimiento de la normativa vigente en nuestra comunidad autónoma es importante

no sé a mí la cuenta de la vieja no me dan los mismos datos

ciento cinco personas y estamos pidiendo un tercio más inspectores

de la plantilla vale y en cuanto al plazo de un año bueno

es demasiado concreta más también que su iniciativa

o tengo ahora aquí pero en el menor tiempo posible o algo así

la razón para no negociar yo creo que habríamos llegado a algún acuerdo estoy segura de ello y luego al portavoz

lo mismo le digo que si el problema era que si ustedes están de acuerdo también en pedir la transferencia

que podríamos haber negociado yo ya sé que en seis meses no se va a conseguir la

lo que pedimos es que en seis meses el gobierno vasco diseñe una hoja de ruta para solicitar y para conseguirlo eso es lo que pedíamos en nuestra enmienda por supuesto que no

bueno viendo que nuestra iniciativa no se va a llegar a votar y que en el objeto de la iniciativa

ampliar la plantilla de la inspección de trabajo y

se consiguió enhorabuena gran éxito del nacionalismo vasco y de sus amigos los socialistas resultado que todo está peor que antes esta es la realidad

la transferencia se realiza por motivos políticos por motivos propagandísticos serio y riguroso de manera precipitada sin planificación así es como se lleva a cabo esa transferencia y la propia asociación de inspectores así lo dice si ustedes han tenido la posibilidad de reunirse una nueva chapuza cómo estamos por lo tanto hoy peor que como estábamos hace tres años con lo cual

que no es cuestión de tener cuantas más competencias mejor sino que sobre todo las que tengamos se puedan ejercer bien y el resultado es evidente cuál

no sé si leyeron ustedes la nota de prensa de la asociación de inspectores habla de auténtico desastre organizativo que es imputable directamente a los más altos responsables de este gobierno organizativo la propia asociación de inspectores habla de

y habla del desmantelamiento progresivo y sistemático de la inspección de trabajo y seguridad social en el país vasco no lo dice upyd lo dice la propia asociación de inspectores

para llevar a cabo su trabajo este es por lo tanto el resultado y esta es la gestión que está llevando a cabo este gobierno vasco esta es por lo tanto la realidad

falta de efectivos en todos los territorios falta de estructura directiva intermedia falta de coherencia y claridad en las relaciones con la inspección estatal y en la propia organización

de inspectores que incluso amenaza con la posibilidad de poner en marcha una huelga

dejen de aburrirnos con sus debates en relación a nuevas transferencias que supuestamente siguen pendientes

vamos a ejercitarlas correctamente este es el asunto por lo tanto señores del gobierno actúen han pasado más de tres años los inspectores están indignados

correctamente ya digo la transferencia efectivamente se ha logrado se logró resultado nefasto y ahora mientras tanto en fin en lugar de

hay que pedir nuevas transferencias en fin un verdadero disparate eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria ruiz andrea zurea da hitza sí presidenta gracias desde

señor aiartza no quiera minimizar la responsabilidad del gobierno llevan ustedes

para justificar lo que hoy es un hecho que el servicio se está prestando de manera deficitaria y es su responsabilidad la responsabilidad del pnv

he dicho que no iba a poner la lupa puesto que íbamos a coincidir en la votación con la propuesta de la señora sánchez en

pero claro de ahí a que usted en su intervención de soslayo quiera hacernos creer que hay más responsabilidad de la que en realidad hay en el gobierno de españa a la hora de que esto

más elegante ya que no ya que nos hemos querido

en la responsabilidad que tienen ustedes una vez que han asumido la transferencia pues con hablar de

dificultades a la hora de materializar lo que ya se ha pretendido hacer pero es que ustedes se comprometieron aquí hace tres meses entonces este debate no tenía que haber tenido lugar si ustedes hubieran hecho su trabajo si hubieran cumplido los compromisos

lo importante hoy hemos llegado a un consenso y esperamos que esta propuesta sea un impulso definitivo para que esto se haga porque es que el tiempo

eso creo y al final todavía todavía

un poco más de humildad reconózcanlo hagan todo lo que tengan que hacer y no intente

me he leído las actas del consejo vasco de inspección de trabajo que es donde se coordinan y el tono y la disposición

señor maneiro usted que atiende tanto al cumplimiento de la ley al cumplimiento de las leyes solicite el cumplimiento

de una ley orgánica del estado del estatuto de autonomía señora ruiz maraña administrativa

nos hablaba de retrasos de incumplimientos parsimonia

de esos treinta y cinco años creo que quince años son de parsimonia de su gobierno en madrid señora sánchez

no se quiere enredar no le gusta mezclar habla de lo que está recogido en nuestro estatuto le vuelvo a decir lo mismo que al señor maneiro el dieciocho punto dos también está

al consejero a que haga uso de toda su competencia de todas sus competencias de esa también y señora zulaica

a mediados de los ochenta en la época esa de la ebullición

donde estaban ustedes cuando el país tanto les necesitaba

y dónde están ahora mismo con ese discurso nos habla de hoja de ruta nos habla de gestión total gestión total de la seguridad social y centrándonos en la inspección y no se para que habla de la gestión global tan amplias como la que nos dicen qué es lo que piensan hacer o lo que pensarían hacer con esta gestión global

de la misma manera que actúan en la inspección en otra inspección

hasta les ha demandado la propia abogacía del estado alegando que ustedes privatizan el servicio público que debe estar en manos de funcionarios aclárese señora zulaika no nos traiga aquí estos discursos debe de hacernos aquí esos grandes puntos dos de las enmiendas hágalo usted a sus alcaldes

cuerpos policiales como la guardia civil que cuentan con un servicio de protección de la naturaleza l seprona cuyas áreas de actuación

el patrimonio histórico la prevención e investigación de incendios actividades cinéticas la pesca continental marítima etcétera no las voy a leer

en el que vienen absolutamente detalladas cuáles son las funciones
y como cometidos fundamentales de dicha unidad isiltasuna mesedez tenemos la investigación para el esclarecimiento de los delitos y faltas la denuncia

la prevención de las conductas contaminantes del medio ambiente a través de la vigilancia y control de actividades potencialmente degradantes la protección del soporte físico natural
el fomento de conductas de respeto a la naturaleza el medioambiente o la protección de especies entre otras llanos andrea mesedez isildu momentu bat

creo que es unánimemente reconocido por lo que lo que venimos a solicitar es que el funcionamiento del servicio que actualmente existe

porque es verdad que en el año dos mil diez y dentro de la sección central de investigación criminal y policía judicial se crea un grupo formado por seis agentes con diversas titulaciones relacionadas con el área de trabajo y con unos mínimos

se ve muy limitada por la multitud de normas de carácter administrativo cuyo conocimiento a veces resulta inabarcable dichas personas tienen estudios relacionados con el derecho con las ciencias biológicas con las químicas y han recibido cursos o cursillos relacionados con el medio ambiente pero nosotros estimamos que se requiere más formación muy importante en los delitos medioambientales

si no se llega rápidamente al lugar de la infracción y se realiza una correcta toma de pruebas esta sección comienza tímidamente como decíamos en el dos mil diez

se ha materializado en dieciocho actuaciones y en el dos mil doce en trece actuaciones por lo tanto vemos que el número de actuaciones en un territorio como es el de la comunidad autónoma del país vasco

escaso y lo de que comienza su actuación tímidamente no lo décimos nosotros la memoria anual de la fiscalía del año dos mil diez

de este grupo señalando también que solo actuaba a impulsos del fiscal y que en ocasiones delegaba la actuación concreta en otras acciones o en otros organismos poco a poco

periódicas entre esta sección de la ertzaintza y los fiscales provinciales segunda memoria de la fiscalía en el año dos mil doce solo en bizkaia se incrementan los asuntos en un ciento veinte por ciento

y se pone de manifiesto la falta de medios materiales y de formación para la investigación en la memoria de dos mil trece se vuelve a poner de nuevo de manifiesto la falta de medios materiales y formación en la ertzaintza para la investigación de este tipo

por lo tanto en las memorias que van en los periodos dos mil diez dos mil trece

para comprender la necesidad de la propuesta que hoy traemos aquí

que la unidad de medio ambiente y urbanismo establece sin problemas relación y calendario de reuniones con las fiscalías de los tres territorios pero en segundo lugar que enseguida se ve que el trabajo de esta unidad

si tuviera más medios de los que tiene en este momento porque la utilidad de la unidad está clara pero esa utilidad puede serlo mucho mayor si se convierte de verdad en un grupo que esté establecido en una verdadera unidad y si se le dan los medios

pone de manifiesto una y otra vez la precariedad de los medios materiales y humanos de esta unidad

sin que la repetición de año tras año de este hecho haya llevado a dotarles de dichos medios y pese al incremento sustancial del número de denuncias a investigar en este último sentido la fiscalía

con presuntos delitos que afectan al medio ambiente y el urbanismo son una importantísima fuente de información

pero vista la escasez de medios humanos y materiales escasez constantes de su origen es evidente se detectan como decía cada vez más presuntos delitos por el trabajo de la unidad muchos otros no pueden ser investigados convenientemente o permanecen sencillamente ignorados así podemos poner un ejemplo no hace mucho la unidad de medio ambiente y urbanismo investigar medio centenar de chatarrerías y otros establecimientos de recogida de materiales

realizó una inspección por sorpresa en diecisiete chatarrerías

que se trabajaba de forma irregular sin permisos y contaminando de diversa forma el medio natural y eso ha sucedido hace menos de cuatro meses y demuestra dos cosas

los delitos aparecen y parece que están extendidos y segundo

no están ahí desde hace poco sabemos que llevan años cometiéndose y años esperando que se investiguen pero lo cierto es que como he dicho al principio en el año dos mil doce trece actuaciones y en el año dos mil trece hemezortzi

un total de doce y el resto se refieren a temas de urbanismo patrimonio histórico o incendios forestales de esas actuaciones dos

de medio ambiente por eso creemos que es fundamental

una verdadera unidad de medio ambiente específica y que cuente con los medios humanos con formación relacionada con dicha materia medioambiental de primer nivel y que cuente con suficientes medios

porque en estos momentos que no haya más hechos investigados a nuestro juicio tiene una causa clara y es esa falta de medios humanos materiales y técnicos

porque los medios dedicados a los temas medioambientales son más que insuficientes son mínimos en muchos casos lo que no puede volver a suceder

nos tenga que avergonzar señalando como lo hace cada año en su memoria la ausencia de formación y medios

es difícil entender por qué no se ha reaccionado antes porque como decía los delitos medioambientales no son una cosa que surge

pero bueno como se suele decir más vale tarde que nunca porque nuestro medio ambiente necesita y porque el trabajo

y por lo tanto nos demanda que para alcanzar muchos más éxitos esos medios sean complementados

y de que deberíamos de ejercer competencias que en este momento no ejercemos pues bien

para encargarse de los ilícitos medioambientales dotémoslo de los medios materiales

pasa por ello por dotar de formación específica de primer nivel por medios

hemos visto que el plan formativo de la academia de policía de arkaute para el año dos mil quince uno de los ejes es el medio ambiente

de cursillos más allá de formación necesita también medios humanos

para los que pueda desarrollar la labor en los ilícitos medioambientales no solo como digo hay que dar cursos formativos sino que hay que actuar ya dotando de muchos más medios ello es lo que solicitábamos finalmente hemos llegado a una enmienda de transacción que lo que pedimos es que se consolide y que adquiera el carácter de estructura definitiva

que se dote de mucho más personal que se dote de muchos más medios

horrela esaten duelako asimismo dada la ausencia de formación y medios materiales

se tuvo como solución que seguiría siendo ura quien tomara las muestras correspondientes en caso de vertido beraz nahiko argi geratzen da

legebiltzarburu andrea lehendakari legebiltzarkideok arratsalde on guztioi la agresión al medio ambiente es consustancial con la propia existencia del ser humano en la tierra

chernobil bhopal seveso en el contexto internacional doñana prestige en españa son ejemplos clarísimos de descontrol y de sus consecuencias para la humanidad

hechos provocados por el afán de consumo del ser humano y del descontrol más absoluto

existen y se incrementan constantemente por eso están perfectamente tipificados concretamente en españa en el código penal en su título dieciséis recoge

las competencias en materia de control medioambiental corresponden a la comunidad autónoma de euskadi aunque también los territorios históricos y los ayuntamientos tienen sus propias competencias a la ertzaintza como policía integral vasca le corresponde la investigación y persecución

tiene facultad para actuar ante la evidencia o sospecha del delito no obstante la importancia y las características especiales de este tipo de delitos requieren también del concurso

por eso en mayo de dos mil diez el entonces consejero de interior el socialista señor ares anunció en comparecencia en esta cámara

especializados en la investigación persecución y esclarecimiento de delitos contra el medio ambiente este grupo se integró en la división de seguridad ciudadana y recursos operativos para ejercer su labor por propia iniciativa o a instancias de las diferentes comisarías o unidades cuando fuera necesario en virtud de la importancia o complejidad

en la conferencia que he referido se dejó constancia que aquella decisión

que requería su desarrollo lo cierto es que en esta legislatura

en relación con los ilícitos medioambientales es la misma que cuando se creó el equipo mencionado el equipo

por lo tanto consideramos que hay que incrementar los recursos humanos

y mejorar la dotación de sus medios técnicos para conseguir un desempeño

en este sentido también creemos imprescindible incrementar la colaboración con las administraciones forales y locales y la coordinación con la fiscalía correspondiente como ya se ha dicho

estas cuestiones y que espero que tenga una amplísima mayoría de refrendo en esta cámara muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna

decíamos hoy estamos en un tema que nosotros consideramos que es innecesario como luego con datos y en la propia justificación de la pnl original presentada por el grupo popular se aludía precisamente

se aludía a las actuaciones de esta unidad de medio ambiente que ya existía

en aquel pleno consecuencia un mandato parlamentario de noviembre de dos mil nueve más concretamente de la proposición no de ley setenta y cinco barra dos mil nueve

con fecha seis de octubre del dos mil diez el entonces consejero de interior señor ares informó en respuesta a una pregunta parlamentaria de la creación del grupo de investigación de delitos contra el medio ambiente con la creación del área de medio ambiente y urbanismo en la entonces división de policía de lo criminal

el mandato parlamentario del dos mil nueve la denominación de grupo

la división lo cual entendemos que es desproporcionado y excesivo en esta materia por tanto la pnl original en definitiva parece que cuestiona

señor ares por considerarlo insatisfactoria y lo hacía aludiendo a lo supuestamente pobres estadísticas de los años dos mil doce y dos mil trece que aquí se han mencionado trece actuaciones en dos mil doce y dieciocho en dos mil trece

a la memoria de la fiscalía de la comunidad autónoma del país vasco del dos mil ocho que se mencionaba precisamente por el señor maeztu en aquel pleno de noviembre del dos mil

la memoria del dos mil doce de la fiscalía coordinadora resalta la incorporación de referencias positivas a las secciones de las policías autonómicas especializadas en medio ambiente

a las memorias de las fiscalías de álava y gipuzkoa en relación a la ertzaintza y este no es un planteamiento que lo diga el pnv ni que lo diga el pp lo dice

además aquí se ha hecho referencia a la memoria de la fiscalía de la comunidad autónoma del dos mil catorce vemos que hay interpretaciones distintas o cada uno coge lo que más le interesa y vuelvo a decir que no es una interpretación partidista no

pero sí que me voy a quedar con la conclusión que es que desde la fiscalía en esta memoria del dos mil catorce

destacando la colaboración la cooperación coordinación en esta materia sí voy a leer y voy a hacer referencia

respecto a la protocolización de la recogida de muestras de agua por la agencia ura

de este área de medio ambiente a fin de levantar el acta la fiscalía en esta materia apunta a la falta de capacitación y medios propios de la ertzaintza sí señor maeztu para esta toma de muestras que bien podría solucionarse mediante la formación pero también que en ningún caso implica merma de la eficacia de la investigación actuar en colaboración con otros expertos

sea inspectores de medio ambiente etcétera y señora llanos decía respecto a la referencia que ha hecho a sonrojar y a avergonzar por estas referencias de las memorias que usted ha utilizado de las memorias de las fiscalías sí decirle también

sí hace mención en su última memoria a la carencia de medios y plantilla de las propias fiscalías especializadas y algunos fiscales delegados

la carencia de medios por parte de seprona así como de la unidad de delitos urbanísticos de la guardia civil por tanto sonrojar no sé quien se tiene que sonrojar

deriva de denuncias de particulares de asociaciones de ecologistas de la inspección medioambiental de los organismos reguladores del agua la pesca o los servicios de montes además

realmente nosotros creemos que no hay la percepción de que exista y máxime en el ámbito medioambiental una cifra oculta de delitos que no son denunciados que los datos de la fiscalía se desprende que los delitos medioambientales y contra el urbanismo en euskadi son los que son

planteamiento del señor unzalu no implicaría que aflorase mayor número de ilícitos sobre todo porque la motivación

en una sobresaturación de los recursos especializados por lo tanto

además de ponerlo de manifiesto los informes de la fiscalía y en su argumentación dice que achaca las estadísticas a la escasez de personal

a la limitación de la formación de los miembros de dicha área sin embargo

tal información perdón no tiene en cuenta la organización prevista

que solo seis ertzainas cinco y un jefe de operaciones se dedican a cuestiones medioambientales

la investigación de los ilícitos de estos y de todos los demás se lleva a cabo en los tres niveles de la organización comarcal territorio histórico y central apoyándose unos niveles

y la necesidad de coordinación y en el nivel central existen grupos de investigación especializados entre los cuales se encuentra esta área que investiga por sí misma determinados delitos complejos y coordina y da apoyo a la investigación de los delitos medioambientales y urbanísticos

algo parecido a lo que el señor consejero de interior en aquel momento señor ares manifestó

entendemos que la decisión organizativa adoptada en la pasada legislatura

se encarguen de la coordinación de las investigaciones así como de los casos que tengan que asumir para realizar ellos directamente la investigación se trataba de reforzar el trabajo como especialistas

al hilo del ejemplo que ha puesto la señora llanos del supuesto del empleo de las chatarrerías

y en cuanto a policía integral puede haber actuaciones concretas

tanto de investigación como seguridad ciudadana para hacer las investigaciones oportunas en cuanto a la formación que es el otro aspecto al que hacía referencia bueno en los planes de formación de la academia vasca de policía se incluye actividades formativas medioambientales destinadas a los agentes en general y a determinadas secciones como por ejemplo en el plan de formación dos mil catorce ya realizado y también

en la academia reciben una formación básica también en lo que hace referencia a la lucha contra delitos medioambientales y como ponía de manifiesto la señora llanos uno de los compromisos transversales en la planificación de dos mil quince en la academia vasca de policía de este año será el medioambiente en este campo la academia incorpora cursos para la ertzantza

los cuerpos de policía local sobre la patrulla policial en el entorno rural en el caso de los cursos para el área de investigación de las comisarías de la ertzantza se incorporan cursos

ante incendios y el plan de defensa nuclear radiológico biológico y químico a la práctica totalidad de los colectivos mejorando también la formación de la sección de medioambiente de miñones

finalmente creo que ha ido usted directamente al grano ya que ha empezado su exposición

parece querer sustituir el área actualmente existente cuyo ámbito es el mismo

por otra exclusivamente dedicada a cuestiones medioambientales tomando el modelo

que no es propiamente un servicio de investigación criminal y policía judicial sino que ejercita todas las labores de vigilancia además de lo que es propiamente investigación sin embargo en nuestra comunidad autónoma como bien saben ustedes tanto el partido popular como bildu

arquitectura institucional establece que la vigilancia y protección del medioambiente y la conservación de la naturaleza están singularmente atribuida a otros sectores de la administración autonómica foral o local las cuales ya disponen de personal destinado a tales labores

hay que tener en cuenta el reparto competencial entre las distintas instituciones

las cuales cuentan con los medios de prevención y vigilancia correspondiente a las mismas

que puedan ser constitutivas de delito colaborando así mismo la investigación por lo tanto el modelo seprona no es válido en euskadi ya que el reparto

además en el ámbito estatal las fiscalías especiales de medioambiente y urbanismo deben tratar además de con seprona con las unidades de delitos urbanísticos por separado mientras que aquí

se amolda al ámbito de actuación de los fiscales especializados por lo tanto no hemos firmado la enmienda transaccional que por cierto se nos ha ofrecido el firmar esa enmienda transaccional

era más coherente ya que plantea sí formación continua

e incrementar la colaboración y coordinación con la fiscalía con las administraciones forales y locales

nos abstendremos a la enmienda transaccional eskerri asko eskerrik asko zorrilla jauna

gracias señora presidenta la verdad es que no pensaba que iba a tener que intervenir en la réplica

todos de acuerdo hombre yo he puesto como ejemplo el seprona porque creo que es un servicio no sé si los fiscales y no me voy a meter porque aquí estamos en la comunidad autónoma del país vasco no sé si los fiscales delegados tienen quejas en su caso

en los órganos pertinentes y que controle el funcionamiento de la guardia civil que hagan las quejas en su caso pertinentes o las peticiones pertinentes pero es un servicio que es por mucho grupos ecologistas

bien valorado y de lo que se trata es de que cuando es bien valorado algo similar se establezca en la policía

de la que sí es competente en su caso para controlar su funcionamiento este parlamento

de la memoria y de que el grupo existía que el grupo existía es verdad y usted lo que ha hecho es leer una frase además que si usted va viendo las distintas memorias muchas veces las memorias son de corta pega

que lo que alaba es la colaboración con la policía autónoma vasca por parte de la fiscalía con ese grupo aparece en todas las memorias si yo no he dicho que haya mala relación

materiales personales y formación reconocidos por los propios agentes reconocidos por los propios agentes que dicen que les falta formación y que tienen

algunas de las investigaciones que tienen que realizar

que yo creo que de lo que se trata es de que tenga medios propios la policía para investigar delitos

que tienen una gran complejidad no necesitan un cursillito dice no es que tienen

a su disposición pero es que no se trata de eso si se requiere una formación específica y se está diciendo que los propios integrantes de ese grupo no tienen la suficiente formación como para pretender que la tengan toda la policía autónoma vasca para auxiliar a ese grupo de unidad medioambiental creo que es eso algo que no se sostiene es que las peticiones reiteradas de mayores medios personales de mayores medios materiales de mayor especialización de las personas que integran ese grupo son reiteradas por parte de la fiscalía se lo he dicho antes y se lo puedo leer

se dice que se tiene que ejercer una labor de criba de las quejas manifestadas por qué se tiene que hacer una labor de criba usted cree que es normal que cuando hay

de criba porque no se pueden investigar todos los casos porque no hay personal suficiente no

debieran de ser investigadas y la policía autónoma vasca debiera de tener los medios personales materiales y técnicos para poder investigar en profundidad todas esas actuaciones presuntamente ilegales porque además es que la propia fiscalía dice que son

no se tendría conocimiento de esas actuaciones presuntamente ilegales y desde luego es bueno que todas las denuncias sean investigadas y también sería bueno que la propia

también pudiera investigar no solamente valerse de las denuncias

o de las denuncias particulares sino que a su vez también pudiera investigar esos ilícitos criminales en medio ambiente y en urbanismo por qué no lo puede hacer porque no tiene suficientes medios que es una unidad da igual cómo se llame unidad división grupo de lo que se trata ese era el sentido de nuestra iniciativa es de que funcione de que sea una estructura consolidada de que tenga suficientes medios

que probablemente trabaja mucho y bien pero que no llega a todo sino que realmente si nos tomamos en serio los delitos medioambientales y contra el urbanismo tiene que estar dotado y por supuesto

la arquitectura institucional de nuestra comunidad autónoma y respetando las competencias

por supuesto que sí pero eso creo que es algo

en la enmienda para que quede claro pero que creo que es algo obvio porque no es más que cumplir la ley y respetar la distribución de competencias que en euskadi existe y la colaboración policial en su caso

forales pero creo que sin medios suficientes materiales y personales llámese como se llame no se va a conseguir el objetivo que se pretende nada más y muchas gracias

baimenarekin jesarlekutik no simplemente para corregir

no de ley de este parlamento el once de dos mil nueve y que el

en mayo de dos mil diez ya vino a este parlamento

instado este parlamento a hacerlo es simplemente para que quede claro que no fue un año lo que se retrasó el señor consejero ares

el diecinueve de mayo de dos mil diez muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna

presidente zure baimenarekin eserlekutik bueno respecto a lo que decía el señor unzalu parte de razón y parte no por decir todo

me refería a una comparecencia que hubo pero me refería cuando

criminal fue en una respuesta parlamentaria del seis de octubre del dos mil diez y el pleno fue el diecinueve del once

no vamos a insistir en la discusión con la señora llanos respecto a la falta de formación y medios nosotros sí que creemos que la formación es necesaria y por eso en nuestra enmienda a la totalidad

le he tratado de explicar un poco la organización nosotros no somos partidarios de una compartimentación excesiva o la creación de compartimentos estancos con una poca flexibilidad en el funcionamiento de la ertzaintza en su conjunto porque creemos en una policía

y a la coordinación con el resto de instituciones que tienen competencias en estas materias respecto a policía integral aquí aludiendo también a bildu

que el concepto no es el mismo respecto a policía integral

más después de haber escuchado las últimas declaraciones de su portavoz sí también vemos que

no me niegue que ha sido lo primero que ha hecho y que su intención es

fruto del reparto competencial y que está bien valorado por muchos grupos ecologistas pues sí está muy bien valorado por muchos grupos ecologistas y hasta por el señor

ha alabado al modelo seprona de la guardia civil yo no sé si en ese

le confunde el traje de la guardia civil míreselo señor maeztu eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna